es la que puede permitir que se devalúe de manera brutal las condiciones laborales de la clase trabajadora de este país y creemos que defender el marco vasco de relaciones laborales puede ser

por casi dos tercios de los parlamentarios y parlamentarias una causa extendida y común del conjunto de la sociedad vasca porque nos llenamos la boca uno y otro día

las consecuencias de la crisis se manifiestan de diferente manera de la que se manifiestan en el estado español solo atendiendo a esa consideración tendría sentido defender un marco vasco de relaciones laborales porque

que desde aquí se podría entender cuáles son las necesidades de ese tejido productivo para revitalizarlo cuáles son las necesidades de los trabajadores y de las trabajadoras para defender sus derechos incluso también para los que defendemos la existencia de un marco autónomo de lucha de clases tiene sentido el marco vasco de relaciones laborales porque nuevamente en estos días se ciernen sobre nosotros y nosotras nuevos nubarrones o negras tormentas que decían otros ya que a modo de impacto sucesivos y esto lo define con mucha

lo que se pretende es dejar sin capacidad de reacción a una sociedad convulsionada y congestionada por el temor a perder su empleo su vivienda sus derechos y finalmente su dignidad todo en aras a las necesidades del mercado cómo se puede activar el consumo nos preguntamos bajando el poder adquisitivo de los y las trabajadoras un veinticuatro por ciento en los últimos años por qué no y en este caso

que eleva sustancialmente las condiciones laborales y salariales de los y las trabajadoras pero como decía esas negras tormentas que nos vienen

que también amenazan con llegar a nosotros y a nosotros a euskal herria muy pronto y no nos sirve y ya lo digo desde aquí que ayer se haya firmado un convenio entre la ceoe y los sindicatos comisiones obreras y ugt no se pone otra cosa que plazo a la ultractividad y ese es el gran problema porque cuando la clase empresarial insiste en que no va a hacer dejación

que les da todas las herramientas a ellos para desproteger a los trabajadores y trabajadoras

un ganar tiempo que en cualquier caso no cambia lo sustancial de la reforma laboral y esa reforma laboral

y como el límite de la ultractividad lo único que hace es debilitar las posiciones de negociación de los sindicatos

de los pueblos y naciones afectados por dicha reforma laboral es desde luego muy evidente que con menos derechos laborales y con menos protección social y eso es lo que estamos sufriendo también aquí

que se encuentran en una mayor desprotección de la que se encontraban antes de la reforma laboral

o vayan a alargar durante unos meses la vigencia de la misma

y porque esa ultractividad cuando finalice dejará sin efecto lo pactado en los convenios

lo pactado en esos convenios por los empresarios y lo que es peor sometiendo a todos esos trabajadores

que con esta nueva reforma laboral dan un paso más un paso muy importante todo hay que decirlo en aquello que llevan buscando desde hace mucho tiempo que es el modelo ideal de desprotección social y laboral

efectiva hacia los y las ciudadanas hacia los y las trabajadoras y comprenderán que para una formación política que cree en la intervención del estado en la economía esto es algo

de lo razonable y desde luego de lo necesario para los y las trabajadoras no nos parece que sea progresista no nos parece que sea un avance social desproteger y despojar de derechos

para someterse a los dictados o a las necesidades del mercado de la economía global eso ya se hacía hace muchos siglos y nadie en la edad media cuando existían los esclavos o los siervos se atrevía a decir que ser eso era un síntoma de progreso porque no nos engañemos el fin de la ultractividad por mucho que se aplace de los convenios y la imposición del arbitraje obligatorio que esa no se ha tocado

del reino de españa están dispuestos a pagar a una clase dominante la empresarial que tiene más poder e influencia sobre ellos que la inmensa mayoría de los ciudadanos sobre el poder público cuando debiera ser al revés y desde nuestro punto de vista no se trata de conjeturas o de hipótesis ni siquiera de juicios de valor por parte de este grupo de euskal herria bildu con mirar las declaraciones de los diferentes portavoces de adegi cebek

para entender que lo que quieren es imponer su voluntad minoritaria a costa del sacrificio

señalaba estos días que en ningún caso renunciarán a la aplicación de la reforma laboral aprobada por el gobierno de españa así pues la prórroga es solo un recreo un tiempo muerto

con las condiciones laborales que existían en los convenios todavía vigentes porque los consideran que están inflados con respecto a las necesidades del mercado y a lo que el mercado o los empresarios pueden ofrecer es decir

y nosotros nos preguntamos y creo que esto es muy sencillo cómo se puede incentivar el consumo cómo se puede promover la activación económica de nuestro tejido

si lo que hacemos es castigar a la clase trabajadora devaluando sus condiciones salariales

que trabajen más y que ganen menos cómo se puede hacer eso acaso alguien piensa que se puede mediar intermediar o negociar

porque conviene recordar hoy que en esta cámara en el monográfico de empleo se mostró el rechazo a la reforma laboral

vasca y del estado español no dudan en querer aplicar y claro si tienes a una de las partes de esa supuesta negociación con una voluntad clara

de aplicar la reforma laboral incluso aceptando alguna prórroga pero de aplicarla finalmente cómo puede uno pretender que este gobierno

decía confebask o la secretaria general para ser más exacto que los sindicatos rechazan la reforma laboral para que se les devuelva la llave de la negociación colectiva algo que la patronal vasca no va a hacer ni puede hacer ese es el debate de fondo es decir

otorga a la clase empresarial y a los gobiernos que quieran seguir los dictados de la clase empresarial la legalidad para llevar a cabo esas reformas nadie lo duda es así pero es legítimo y este no es un debate que surja ahora este es un debate que ha surgido siempre en la historia de los pueblos cuando las leyes son injustas y atacan directamente a la mayoría de la población como en este caso que nos parece que lo hace de forma evidente a la clase trabajadora

que nosotros optamos dentro de esa confrontación o dentro de esa

de negociación o de reequilibrio social por la confrontación no nos parece que el sindicalismo de concertación el sindicalismo que busca las medidas paliativas aceptando que su posición no es una posición de fuerza sea la mejor opción creemos que es el momento de confrontar y que es el momento de que la gran mayoría que son los trabajadores y trabajadoras de este país de euskal herria

que son determinada clase empresarial de este país que no pueden imponer sus deseos por mucho que tengan la capacidad de promover las leyes que los gobiernos necesiten sacar adelante para seguir contentando sus deseos o sus intereses conviene recordarle a confebask

su rechazo mayoritario a la reforma laboral en ese pleno monográfico de empleo se trata por tanto de que este parlamento y el gobierno de la comunidad autónoma vasca hagan algo coherente y concreto con dicha proclamación de rechazo a la reforma laboral

en todo caso habrá que señalar que confebask con esas declaraciones actúa en sentido contrario de lo que piensa la mayoría de esta cámara se dice muchas veces que hay un grupo que es veintisiete de setenta y cinco también hay otro grupo que es veintiuno de setenta y cinco y que por tanto suman cuarenta y ocho de setenta y cinco

que son dieciséis de setenta y cinco que también se ha mostrado contrario a esta reforma laboral una gran mayoría a la que confebask pretende desoír agarrándose a la legalidad pero desde luego carece de mucha legitimidad arestian

no la emulación de ningún modelo sudamericano latinoamericano ni de ningún modelo de asía

si estamos aquí es porque hemos aplicado esas políticas por tanto seguir manteniendo esa lógica de políticas es

razonable como tener que decirle a la ciudadanía de este país que van a tener que seguir sufriendo las consecuencias de esta crisis sistémica de esta crisis económica y financiera sobre sus espaldas no

defendemos que hay que blindar derechos y recortar privilegios

a líneas políticas que determinan que hay que esquilmar derechos para preservar privilegios

las políticas y reformas laborales y conviene recordar que han sido más de cuarenta y cuatro desde mil novecientos ochenta y seis

que hoy no nos evitemos ante una situación dramática que supone que tenemos una tasa de desempleo superior al dieciocho por ciento o rondando el dieciocho por ciento con picos superiores

no voy a hacer el desglose de cómo afecta a las mujeres las grandes olvidadas del sistema

aquellas que se ocupan de los trabajos más precarizados y que ven como se vuelven a reprecarizar sus condiciones e incluso se las insta al retorno al hogar no voy a hablar de los jóvenes y de cómo tienen que marcharse de este país para buscar mejores condiciones de vida en otros lugares no voy a hablar de los mayores de cuarenta y cinco años que se encuentran ante un panorama no ya incierto sino negro para reincorporarse al mercado laboral o ni siquiera de los pensionistas que eran la gran joya de la corona que nadie iba a tocar pero a quienes se les devalúan constantemente sus prestaciones

la que el empresario decida poner sobre sus cabezas cuando les amenace con aceptar sus condiciones sus nuevas condiciones laborales o implantarles el salario mínimo interprofesional

no creen que solo este dato justifica un cambio de rumbo un plan de emergencia y un plante

tenemos que decir que esta reforma laboral desplaza a los ámbitos de negociación hacia el estado no creen acaso que esto es un claro ejemplo de recentralización que ignora y desprecia nuestro autogobierno incluso nuestra especificidad porque esta reforma

y sabrán ustedes señorías que basta con que argumenten una pérdida de ingresos sobre sus previsiones durante al menos dos trimestres para que puedan acogerse a la reforma laboral y proceder

no significa esto un ataque directo a los sindicatos y su capacidad de acción en la defensa de los derechos de la clase trabajadora

es sí por eso entendemos y compartimos la demanda que va a hacer salir a la calle el treinta de mayo a decenas de miles de personas en este país y por eso entendemos

además que porque se movilizan son conscientes de una cosa que decía una política alemana y no estoy pensando en merkel sino en rosa luxemburgo que solo aquel que no se mueve no siente sus cadenas probablemente porque los sindicatos

porque los movimientos sociales vascos se mueven sienten sus cadenas y porque sienten sus cadenas quieren romperlas por eso se movilizan por eso hacen huelgas y por eso defienden los derechos laborales y sociales

muchas gracias presidenta buenos días a todas y a todos vamos a votar en contra de la moción planteada por
eh bildu porque lo que pretende perjudica o perjudicaría claramente

y votaremos a favor de nuestra enmienda mucho más favorable mucho más positiva a los intereses del conjunto de los trabajadores

los tres primeros puntos de la moción planteada por eh bildu son declaraciones platónicas de imposible cumplimiento ni el gobierno vasco puede blindar los convenios

hacer nada para ello ni puede mantener la ultractividad de los mismos ni el gobierno vasco puede prohibir los arbitrajes lo que pretende eh bildu es que el parlamento pida al gobierno vasco una carta a los reyes magos por irreal e imposible lo que eh bildu pretende y así lo deja claro en su moción más allá de los discursos habituales del señor matute construcción del marco propio de relaciones laborales no un marco de relaciones laborales sino un marco propio distinto diferente

y peculiar y nosotros queremos romper estas cadenas de insolidaridad de particularidad de peculiaridad y por lo tanto

nuestra enmienda un marco donde los derechos de los trabajadores que es lo que defiende eh bildu sean distintos en lo básico

y europa es curioso cuando estamos sosteniendo cuando estamos defendiendo que la construcción europea supone una europa en lo económico pero no en lo social y por lo tanto se debería plantear una europa social eh bildu pretende una multiplicación de marcos de relaciones laborales

equivocación en nuestra opinión la pretensión de eh bildu supone supondría una traición clara

ya que una multiplicación de marcos de relaciones laborales dentro de un mismo territorio económico traería consigo deslocalizaciones diferentes derechos para los trabajadores la división de los mismos derechos sociales de imposible coordinación insostenibilidad de sistemas de protección social de pequeños ámbitos y un largo catálogo de perjuicios para los trabajadores

necesitan fortalecer su posición su solidaridad necesitan más unidad y menos desunión necesitan menos diversificación no es el momento creemos que nunca lo será

eh bildu y otros la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras necesita más unidad más solidaridad

más coordinación en la lucha por el objetivo común de defensa del modelo social

y menos parcializar los marcos de relaciones laborales en territorios cada vez reducidos en territorios cada vez más pequeños o más limitados esto no lo necesitan en absoluto los trabajadores defender tal cosa es atacar a los trabajadores defender tal cosa es perjudicar los intereses de los trabajadores por lo tanto lo que hace eh bildu con su moción es atacar a los trabajadores es perjudicar los intereses

de los trabajadores ya digo se necesita más unidad y más solidaridad

entre todos ellos al margen del objetivo que la moción tiene

y sus consecuencias para hacer planteamientos de insolidaridad nacionalista upyd sí considera que la última reforma laboral y las anteriores

un ataque a la negociación colectiva a los agentes sociales y suponen una

de las relaciones laborales que nosotros hemos venido criticando de manera contundente y clara en los últimos meses e incluso en los últimos años en ese sentido consideramos que la negociación colectiva no se defiende del diálogo social sino profundizando en la propia negociación colectiva y para ello además de las acciones que los agentes sociales hagan defendiendo su carácter de interlocutores y su capacidad contractual corresponde a los poderes públicos ayudar a esa tarea propiciando lugares de encuentro y potenciando social en ese sentido es particularmente rechazable el cuarto punto de la moción ya que pretende reiterar lo peor de la normativa socio laboral vasca

consistente en que para alcanzar un acuerdo este ha de ser tomado por conformidad de la mayoría de cada ámbito lo que suponía un derecho de veto para algunos y ha llevado a la inoperancia

si hay organizaciones sindicales que rechazan el diálogo social y la negociación colectiva

lo que no pueden pretender es la desaparición ni del diálogo social ni de la negociación colectiva es decir la irresponsabilidad de algunas organizaciones no debería obligar a la irresponsabilidad de todas ellas por todo esto rechazamos contundentemente la moción

nuestra enmienda nuestra enmienda lo que propone es instar al gobierno vasco a que con el objetivo de propiciar la defensa de los convenios colectivos el mantenimiento de los derechos laborales

se potencie y propicie el diálogo social en el país vasco donde puedan participar los agentes sociales sin exclusiones gracias eskerrik asko

gracias presidenta señorías quiero empezar mi intervención felicitando a los sindicatos comisiones obreras

que va a permitir que no decaigan los convenios colectivos en la fecha umbral que se había puesto del siete de julio alejando de momento

afortunadamente esto ha ocurrido a pesar de que no tenemos marco propio de relaciones laborales señor matute

que yo esperaba con mucho interés porque esta apelación al marco de relaciones laborales la llevo oyendo de tiempo atrás y yo esperaba que hoy usted me explicara exactamente en qué consiste eso porque tengo para mí que estos es de nuevo uno de esos fetiches semánticos a los que tan acostumbrados estamos por estos pagos

era reaccionario y era no sé cuántas cosas más el diálogo cosa que por otra parte

para buscar acuerdos para alcanzar consensos y para resolver conflictos sin embargo usted ha desgranado y ha hecho un diagnóstico de la situación que no podemos por menos que compartir que duda cabe que la realidad que vivimos

todo el tiempo de su exposición hoy y en otras ocasiones pero no nos dice exactamente qué es el marco de relaciones laborales y créame

eso exactamente porque también tenemos para nosotros que euskadi cuenta con instituciones propias

buscar vías de acuerdo y de entendimiento entre las partes

que en ese hipotético marco de relaciones laborales la clase empresarial actual fuera otra distinta o que fueran a plantear cuestiones distintas o que no se quisieran acoger a la legislación que le sea de interés como los trabajadores obviamente

más protectora de los derechos entonces solo puedo deducir

su propuesta de marco de relaciones laborales a partir de lo que trae su moción y claro su moción y yo le felicito al señor

sigo diciendo que nosotros no lo entendemos muy bien y solo a partir de las propuestas que usted hace podríamos deducir en qué consiste

usted empieza diciendo que el gobierno vasco tiene que actuar de intermediario para blindar los convenios

dos partes ustedes en qué parte están están en alguna porque si están en la confrontación y no en la concertación es que no están en ninguna de las partes por lo tanto parece ser que el gobierno vasco

que ustedes representan hoy aquí en segundo lugar dice

propuesto es que las instituciones sean insumisas que no acaten la ley ley que a nosotros tampoco nos gusta créame entendemos perfectamente que todo este asunto de la reforma laboral

merece todas las calificaciones que usted ha dicho y algunas más seguramente pero nosotros defendemos que las reglas del juego la legislación incluso aunque no nos guste

un esquema de comportamiento político y ciudadano entonces apelar a que las instituciones

como modelo daría una cierta inseguridad jurídica la propuesta que ustedes hacen

que yo creo que dice bastante de sus convicciones democráticas vamos a ver las organizaciones sindicales los agentes sociales tienen derecho

que les parezca pertinentes pero de ahí a pretender que

su aquiescencia o no tiene que vincular a quien no está de acuerdo es decir que

modelo y de hecho así ha venido funcionando durante un tiempo

muchas veces las posibilidades de llegar a acuerdos luego dicen otra cosa que yo creo que también es un problema de error conceptual porque dicen que es que

solo sirven los términos que se plantean para legitimar el modelo económico pues no hombre los modelos económicos son modelos teóricos

en base a diferentes variables sí la econometría luego también cabe el constructo social plantear como una construcción social realmente

pero claro haría falta conocer cuál es el suyo porque no basta solo con plantear y negar

todas las injusticias que el sistema origina que no son pocos pero hace falta también plantear propuestas

viables que sean practicables a partir de los hechos existentes porque como digo los modelos económicos

lo que buscan es en un momento dado y en función de los fines que se persiguen entender

dinero distribución y en función de los fines previstos

la legitimación es un concepto de teoría del derecho de la ciencia política de la filosofía la economía surge como consecuencia de fuerzas que están en juego y

un lugar de encuentro donde efectivamente las discrepancias existen de origen y donde se trata de poner

para tratar de ver si es posible ante los hechos existentes ante las amenazas potenciales de buscar esa posibilidad de acuerdo para que los intereses en juego puedan conciliarse

ese es el terreno de la política porque ustedes plantean la confrontación como

de la concertación nosotros creemos que la confrontación sigue siendo un elemento importante de disuasión

pero plantear la confrontación despreciando la concertación nos parece un poco reaccionario

dónde quedan los trabajadores dónde quedan los trabajadores dónde se ha estado ahora que se define tanto la negociación colectiva durante estos años

dónde se ha estado qué se plantea con el derecho de veto que haya colectivos de trabajadores que por una cuestión de segregación ideológica no puedan tener posibilidad de defender sus planteamientos o de buscar acuerdos si creen necesario porque una mayoría más representativa entiende que ellos son

nosotros sinceramente no podemos estar de acuerdo con eso señor matute entendiendo perfectamente

puede estar presente o no estar presente nosotros no vamos a censurar eso porque al fin y al cabo eso forma parte de la libertad sindical faltaría más pero lo que no podemos apoyar es que

que otros colectivos otros grupos de trabajadores con otras perspectivas de su lucha de clases se queden orillados porque una mayoría

y vamos a apoyar lógicamente la enmienda nuestra que está en la línea de la proposición no de ley que se aprobó

instando al gobierno a que lleve a cabo sus mejores oficios para convocar la mesa de diálogo social entendemos que lo está haciendo

a citar a todas ellas pero siendo público y notorio que algunas desde luego son resistentes y son resistentes entre otras cosas porque parece que les va mejor dejar a los trabajadores con mucho discurso de verbo muy radical pero finalmente en esa situación de indefensión termino diciendo que menos mal que de momento fuera del marco de relaciones laborales propio

de relaciones laborales que facilite el equilibrio entre los intereses de trabajadores y empresas la cultura del diálogo y negociación permanentes entre los agentes sociales debe constituir el eje de las relaciones laborales en euskadi bilduko ordezkariak

eta kamera honen babesa izan zuen parlamento vasco insta al gobierno vasco a trabajar junto con los agentes económicos y sociales en la consolidación de un marco vasco

que sea fruto del diálogo social y que facilite el equilibrio entre los intereses de las personas trabajadoras y las empresas vascas eta beste hau

el parlamento insta al gobierno a exigir la competencia plena sobre la seguridad social y a impulsar el marco vasco de relaciones laborales beraz

avalan nuestra firme apuesta y trabajo a favor de un marco vasco de relaciones laborales por lo tanto las propuestas y actuaciones encaminadas a lograr y mejorar

con el apoyo de euzko abertzaleak siempre que dichas reivindicaciones se hagan respetando la normativa en vigor hemos debatido varias iniciativas en este parlamento

el incumplimiento de artículos o normas en vigor cuyo contenido no comparten nuestro grupo como bien saben no apoya la insumisión a la legalidad vigente

las leyes son de obligado cumplimiento si no estamos de acuerdo con las mismas trabajemos por modificarlas por recurrirlas por buscar los resortes legales que eviten su cumplimiento

lo menos lesivo posible para los intereses de los y las trabajadoras vascas en el caso que nos ocupa hoy y segundo por qué se pide la insumisión de leyes en vigor al gobierno vasco y en cambio se acatan en donde gobierna bildu hace poco

quién o quiénes son los encargados de realizar dicha calificación

qué consideración le merece tener que poner la bandera española en sus ayuntamientos

las tres primeras peticiones de la iniciativa de bildu solicitan el incumplimiento de varios aspectos de la reforma laboral reforma laboral que no compartimos en absoluto pero que insistimos mientras no haya un pronunciamiento en contra del tribunal constitucional es de obligado cumplimiento

los representantes de bildu respecto a la solicitud de intermediación del gobierno vasco ha quedado demostrada su voluntad al respecto para evitar en la medida de lo posible

múltiples reuniones con representantes sindicales patronal agentes sociales y económicos para intentar llegar a acuerdos que eviten menoscabar los logros que tras mucho esfuerzo han conseguido los trabajadores y trabajadoras eusko jaurlaritzak bitartekaritza lana egiteko

en el estado se han sentado a hablar sindicatos y patronal para prorrogar durante un año más la entrada en vigor de este aspecto de la reforma laboral

pero aquí hay sindicatos defendiendo una postura maximalista que a nuestro juicio no nos lleva a avanzar que lo único que son capaces de hacer es convocar una huelga general a nuestro entender la situación es suficientemente grave y apremiante

muy cerca para que se sienten a hablar con la patronal y el gobierno vasco está dispuesto a intermediar tal y como lo ha expuesto hasta la saciedad a fin de lograr

echar por la borda los logros que con tanto esfuerzo han conseguido los trabajadores y trabajadoras pero reconociendo que las únicas partes legitimadas para negociar y por lo tanto para establecer las condiciones de trabajo según la normativa en vigor

pero en euskadi en vez de sentarse a negociar a intentar unos mínimos de consenso los sindicatos han convocado una huelga general para el día treinta de mayo aunque hay que reconocer que lab sí que ha mostrado su voluntad por lo menos de sentarse para

de verdad piensan que esa es la forma de paralizar la ultractividad es esta la manera de trabajar por la consolidación de un marco vasco de relaciones laborales

el parlamento vasco insta al gobierno vasco y demás agentes sociales a consensuar unos mínimos comunes para la resolución de los desacuerdos en la negociación colectiva y en el supuesto

el nombramiento sea hecho de común acuerdo entre los representantes de las partes legeak

que adopte el compromiso de conformar la posible mesa de diálogo social únicamente si se cuenta con la conformidad de la mayoría de cada ámbito por tanto

la mesa no se constituirá dicen matute jauna

llamadas a participar en la misma pero el hecho que una de las patas de la mesa parte muy importante no cabe duda no quiera participar no puede impedir que el resto avance

consensos para la mejora de las relaciones laborales de los y las trabajadoras vascas no creemos en una política de vetos consigamos sentarnos acordar por lo menos unos mínimos que nos permitan avanzar la sociedad y situación económica en la que nos encontramos

por lo tanto avancemos en llegar a acuerdos intentemos frenar dentro de la legalidad y nuestras competencias las nefastas consecuencias de la reforma laboral y evitemos

a favor del diálogo social decirle al señor maneiro lo mismo que al señor matute ya debatimos sobre esta cuestión el viernes pasado recibiendo un respaldo mayoritario de la cámara a la iniciativa del diálogo social presentada por el partido socialista y desde eusko abertzaleak también para el señor itxaso entendemos su enmienda va encaminada a pronunciamientos sobre los que ya se ha manifestado este parlamento por cierto a favor pero que evitan entrar al fondo de la cuestión que es el relativo al impulso del marco vasco de relaciones laborales besterik ez eskerrik asko

señora presidenta y buenos días a todos bien la verdad es que

en la iniciativa como tal no figuraba la reforma laboral pues que todo el debate iba a girar sobre la misma era algo evidente que esa reforma llevada a cabo por la ley tres barra dos mil doce y que profusamente hemos debatido en esta cámara iba a volver a salir y cada uno vamos a utilizar los mismos argumentos que en su momento utilizamos

en un momento de crisis y yo no creo como decía el señor matute que esa crisis haya caído del cielo no pero lo cierto es que estamos en un momento de crisis como nunca se ha conocido en una coyuntura

renovar el marco de relaciones laborales necesitábamos un modelo de relaciones laborales descentralizado cercano y con margen de maniobra

si queremos volver a crear empleo necesitamos eliminar esas ataduras que tenía nuestro tejido laboral porque los problemas del mercado laboral español lejos de ser coyunturales se han manifestado como estructurales y por ello

era necesario eliminar la rigidez dotando a nuestro marco de relaciones laborales de la flexibilidad necesaria que permitiese adaptarse a las circunstancias económicas

cuando se salga de la recesión decía recuperar la senda de la creación del empleo con mayor celeridad pero desde luego la filosofía laboral de eh bildu y la que defiende este grupo mantiene serías discrepancias un pilar básico

es la flexibilidad interna de las empresas como alternativa a la destrucción de empleo

mercado de trabajo una estrategia política encaminada a lograr un mercado laboral flexible

más reactivo más inclusivo y más competitivo y no es un concepto que españa se haya inventado es un concepto en el que europa viene trabajando desde hace mucho tiempo

las condiciones laborales a las circunstancias concretas que atraviesa la empresa siempre con la vista puesta en evitar el cierre empresarial que traería consigo la pérdida de empleo con todo lo que ello conlleva y en esa adaptación

no un obstáculo y la negociación colectiva se debe potenciar sí pero se deben también evitar enrocamientos y ello

adelantar la renegociación antes de la finalización de la vigencia de los convenios pero como decía tenemos filosofías laborales muy distintas

mismos argumentos ustedes apuestan por el mantenimiento de un modelo laboral que mantenga los defectos del pasado y que en buena parte son los que nos han llevado de la situación actual y lo que quieren

manteniendo posturas maximalistas a veces incluso en contraposición con los derechos de los trabajadores y quieren mantener ese control porque política y acción sindical están demasiado unidos en este país

y como se dijo aquí hace poco hay muchos partidos políticos que tienen su referencia en determinados sindicatos

en este momento anteriormente eran otros verdad pero ahora

porque evidentemente los sindicatos pierden fuerza con esta reforma y por ello los sindicatos prefieren una legislación laboral rígida

aunque suponga un obstáculo para adaptarse a las condiciones económicas y al cierre de empresa prefieren una legislación que permita bloquear la negociación

prefieren y se lo han dicho aquí más grupos

porque no se dan las condiciones y además de no sentarse piden que la mesa no se reúna

y entre esas condiciones está que en dicha mesa hay que estudiar la modificación del modelo porque según ustedes y los sindicatos nacionalistas el modelo social y económico no es el adecuado y en esa mesa también quieren ustedes plantear

y ahí está el núcleo de sus pedimentos quieren más allá de un cambio de modelo laboral un cambio de modelo de país y como siempre van a contracorriente

sumar empeños apostar por la colaboración ustedes apuestan por la separación

globales ustedes apuestan por el localismo por el ámbito cerrado ustedes y los sindicatos están anteponiendo sus intereses nacionalistas a los intereses laborales

que aquí usted le hizo hace quince días al señor consejero y fruto de esa interpelación ha presentado una moción que no consiste más que en pedir un incumplimiento detrás de otro en eso consiste en nada más

es más usted señor matute señaló que no vale el recurso de que hay que cumplir la ley porque las leyes son una traducción de una determinada voluntad o impulso político entonces según ustedes si un empresario incumple la ley porque la considera a su juicio no justa qué hay que hacer

no se sigue el procedimiento legalmente establecido no que es el intentar cambiarlo simplemente se insta a su desobediencia

las normas injustas no se cumplen eso sí

las leyes las cumple ha rajatabla aunque sea supongo con un disgusto monumental pero se cumplen ya sea la de bandera ya la del límite del déficit la que sea

como supongo ya le digo que con un disgusto tremendo el ayuntamiento de orduña despidió a cuatro empleados empleando argumentos que critica

lo hicieron aplicando el marco propio de relaciones laborales y el nuevo modelo socio económico ese marco

que según ustedes es la panacea solucionadora de cualquier eventualidad y en este punto simplemente voy hacer mías las palabras del señor consejero

en la respuesta a su interpelación nuestro modelo social y económico es compartido con los países más avanzados esos que para muchos son referencias en materias sociales y laborales

y como le decía analizando la propuesta que es esta

para blindar los convenios nos explica cómo también se pide que se adopte el compromiso de mantener la ultractividad claro también

las partes se reúnen aquí que es lo que pretende además la ley que las partes se reúnan que las partes negocien no

el enrocamiento de las posiciones aquí no aquí las partes prefieren la pancarta se dice también que el gobierno vasco

del que ya hemos hablado también en esta cámara fue instaurado como previsión ante la falta de acuerdo de las partes en el caso

y que de esta forma interviniese la comisión consultiva nacional de convenios colectivos para dar solución a la discrepancia este órgano está previsto para aquellos centros de empresas situados en el territorio de más de una comunidad autónoma y en los demás casos

autónomas que si no se constituyen pues evidentemente habrá que ir al comité consultivo nacional pero ustedes no quieren los sindicatos nacionalistas no quieren sentarse para la constitución de ese órgano aquí

autónoma en este momento no lo tenemos pero no lo tenemos por los vetos de alguno nosotros ya dijimos que estábamos de acuerdo porque entre otras cosas estaban previstos en la ley pero su opción

nada porque prefieren la pancarta a la conversación

desde luego no se lo digo yo solo se lo ha dicho toda la cámara

y si alguna de las partes considera a su juicio que no se dan las condiciones y garantías entonces no solo no acuden a la mesa lo cual este grupo considera que es una grave irresponsabilidad sino que además piden que la mesa es decir si yo no voy que no vaya nadie desde luego

el viernes pasado como se lo ha dicho la señora arregi no se lo voy a reiterar aquí acudir a la mesa es voluntario

se reúne desde luego lo consideramos como le decía una grave irresponsabilidad esto es su concepto de negociación

de relaciones laborales los que tanto dicen defender la palabra lo que deben hacer

más hablar y menos imponer más colaboración y menos vetar por ello como no puede ser de otra forma vamos a votar negativamente a su proposición no de norma porque también se lo han dicho aquí

están para ser cumplidas pero ustedes ya sabemos que el respeto a las leyes

los ponen en un papel pero nunca los llevan a la práctica nada más muchas gracias eskerrik asko llanos anderea erantzunen txandan sartuz matute garcía de jalón jaunak dauka hitza

parecía que era un país imposible para llegar a acuerdos y hemos conseguido un acuerdo eh bildu ha conseguido un acuerdo que todos ustedes

en contra de la propuesta de eh bildu en contra de la aplicación de la reforma laboral por criterios de legalidad de respeto a la misma

defendiendo la reforma laboral o por lo menos no haciendo todo lo que está en nuestra mano para impedirla preguntaba la señora del partido popular o señalaba la señora representante del partido popular cuál era nuestra referencia sindical

que entiendo que como antagonistas políticos que somos su referencia ya no sindical sino empresarial

la patronal y probablemente eso tiene que ver con la lucha de clases pero eso sería muy largo de explicar y creo que solo tengo cuatro minutos y ocho segundos luego dejamos para otro día si a usted le apetece pero en cualquier caso en ese debate también sería muy interesante de que habláramos del papel de los sindicatos porque lo que usted plantea no son sindicatos

eso dista mucho de lo que dice el estatuto de los trabajadores y de lo que explica la función social de los sindicatos que también como digo lo podemos dejar para otro debate y ya que habla tanto de flexibilidad espero

no nos haga llegar hasta taiwán o bangladesh en esta flexibilidad laboral para ser competitivos

señala usted y me han señalado más representantes que bildu cumple la ley a rajatabla yo le pediría una cosa

informes a la audiencia nacional instando a nuestra ilegalización porque no cumplimos la ley o porque queremos desobedecerla no sería desde luego muy lógico y señalaba usted orduña que no sé porqué previa que iba a pasar pero antes sí que quiero decir una cosa

con los países europeos más avanzados por qué no entonces hacemos un salario mínimo interprofesional que nos equipare realmente con ellos porque ustedes y yo sabemos que eso no es cierto

del salario mínimo interprofesional que tenemos en esta comunidad que tiene euskal herria y que tiene incluso el estado español pero bueno citaba usted a orduña que era un clásico no sabía si iba a ser usted u otro grupo parlamentario pero era un clásico

que despidan a doscientos cuarenta y dos personas que josé luis baltar

en este país tampoco ha sido no observada que es la de

en procesos que no son demasiados transparentes de eso ustedes son unos maestros josé luis baltar

y por ir con lo que han comentado otras formaciones políticas sí quiero señalar una cuestión

en el texto de la moción luego no tiene por qué extrañarse salvo que no la haya leído y creo que no es el caso entonces como creo que no es el caso lo que creo es que usted intenta desviar el debate vertiendo

una afirmación que no es real y que por tanto es falsa o mentira directamente porque aquí en el propio texto habla de la reforma laboral y las condiciones que establece la moción hablan de la misma ligadas

pero como decía se nos dice que la reforma laboral es mala de hecho

en este hemiciclo en contra de la reforma laboral otra cosa es la vía a seguir nosotros

con los veintisiete de setenta y cinco o con los dieciséis de setenta y cinco

ese yo creo que es el acuerdo que quiere la mayoría de la sociedad vasca ese yo creo y creemos que es el acuerdo que reivindican y necesitan

y la crisis por qué no nos ponemos de acuerdo en eso y ya lo sé

la apelación a la legalidad que no son partidarios de quebrar la legalidad ni ahora ni nunca señor itxaso ni ahora ni nunca ni en este caso ni en otros muchos si es que el tema de la insumisión tuvieron que venir sus señores correligionarios

hacían declaraciones valorativas en positivo de lo que suponía la insumisión pero tuvo que ser el partido popular el que

si no iba dirigida precisamente a que ustedes harían algo que no han hecho nunca lo que sí que pedimos

para los y las trabajadoras es lo único que planteamos y termino con una cuestión se nos acusa de totalitarios y se nos acusa de insolidarios

sean precisamente los mismos que defienden en el estado español que se blinde las condiciones laborales de los trabajadores y de las trabajadoras españolas frente por ejemplo

para defender el ámbito estatal no es bueno para defender el ámbito vasco probablemente porque ahí sí

sí prima una identidad nacional por encima incluso de la identidad de clase eskerrik asko matute jauna

los mismos planteamientos y argumentos que la proposición no de ley que salió adelante el otro día qué ocurre que cuando se plantean iniciativas que tienen los mismos contenidos o las mismas finalidades no vamos a cambiar de planteamientos tenemos que mantener el mismo planteamiento eso es algo lógico y elemental

de centrar el debate en el objeto en el objeto de la propuesta que era el marco vasco de relaciones laborales

y más allá de explicar con detenimiento cuál es la situación que vive la sociedad que es realmente terrible

de las cosas que se proponen concretamente en la iniciativa y claro decíamos que se propone

a la ley pues sí hay leyes que efectivamente no dan ganas de cumplir ciertamente pero es que las instituciones

y de ordenamientos que no permiten porque claro yo estoy seguro que a bildu si en un pueblo donde se instala el puerta a puerta hay unos vecinos que dicen que por aquí tururú

la legalidad no es un becerro de oro al que hay que adorar pero es que la seguridad jurídica es

en qué terreno se mueven y qué es el ámbito de lo permisible y qué no es lo permisible más allá de que nos guste o no nos guste por eso décimos

la naturaleza de las instituciones o de cualquier negocio jurídico no depende del nombre que se le ponga depende de sus contenidos y decíamos que en euskadi tenemos instituciones y tenemos

esas relaciones laborales nosotros no décimos cuáles son los límites

discusiones que se puedan plantear porque las relaciones laborales por definición son precisamente la búsqueda de una armonía si es posible dentro de intereses contrapuestos esto es una cosa elemental

existen esos órganos existen esas instituciones para darle contenido a todo eso como ustedes no explican realmente más allá de lo existente en qué consistiría

y lo tenemos que deducir de sus planteamientos vemos que es desacato a la legalidad planteamiento de veto no crea que yo empleo el término totalitario con afán de menoscabar sus convicciones

se deduce claramente que si un grupo por muy representativo que sea pretende que él decida por él todo pues hombre eso es un planteamiento sí de totalidad

eso es libérrimo siempre y cuando no se pretenda que esas estrategias se impongan a colectivos de trabajadores cuyas representaciones sindicales tienen otros planteamientos

no me negará señor matute que todo este planteamiento se basa curiosamente en que

los que son nacionalistas entonces están dotados de la pureza inmaculada y eso no es así

alguna mención a ello sindicatos de referencia ya sabemos que no solo es lab habrá algunos más también pero hablamos de sindicatos más representativos

sindicato al que yo respeto profundamente por supuesto pero pueda seguir la misma estrategia que sigue ela porque la secretaria general

presupuesto se basa si es que realmente en cuestiones transcendentes parece que tampoco hay acuerdo de manera

permitan ustedes que otras perspectivas otras formas de defender los derechos de los trabajadores aunque no resulten tan genuinas ni tan rodeadas de esa épica que tanto les gusta pero que a la final y a la postre

son eficaces en medio de la dificultad que hay hoy para defender los derechos de los trabajadores que nadie niega las dificultades históricas en las que se encuentran hoy

pero pese a ellos se buscan fórmulas se buscan vías que sean posibilistas y no de enrocarnos en discursos que son muy encendidos que son muy clamorosos y que pueden tener además un prurito

pero que no terminan por llevar a ninguna parte salvo a dejar a los trabajadores finalmente desmovilizados la huelga del día treinta podrá ser un éxito en cifras

eskerrik asko berriz ere legebiltzarburu andrea es verdad señor matute que en su moción sí que se menciona de refilón la última reforma laboral pero también es cierto de refilón lo único que se dice es

pero la moción trata sobre el impulso del marco vasco propio de relaciones laborales y lo cierto que su discurso ha ido más encaminado a criticar la reforma laboral con la que ya le hemos dicho que no estamos en absoluto de acuerdo lo defendimos en madrid cuando se trató esta reforma

sobre estos temas es verdad que no estamos de acuerdo pero que es ley intentemos si no estamos de acuerdo con ella que las leyes por supuesto

intocables pero lo que hay que hacer es si no nos gusta trabajar para modificarla para recurrirla para buscar los resortes legales que existen para evitar que ese incumplimiento o

cree los menores daños posibles a los trabajadores y trabajadoras

en evidencia en muchísimas de nuestras intervenciones que no compartimos con ustedes la desobediencia a las leyes que ustedes además

instan a los demás

a dicha desobediencia pero después acatan

donde gobiernan respecto al tema que nos ocupa del marco vasco propio de relaciones laborales nosotros entendemos que lo que tenemos que hacer entre todos es intentar hablar

sindicatos agentes sociales económicos y el gobierno está dispuesto a intermediar porque esa es su labor para

supone y que además que son de inmediato que van a ser efectivas muy pronto si es que no conseguimos llegar a acuerdos entre todos

en la respuesta a la interpelación del señor matute trabajar por un marco propio de relaciones laborales es tal y como el gobierno está haciendo

comunidad un acuerdo interprofesional entre las partes legitimadas para ello esto es los sindicatos y la patronal trabajando el gobierno para intentar unirles y que se pongan de acuerdo y que se sienten no sé por qué

lo que tenemos claro es que cada uno tiene sus competencias y la competencia para hablar de las relaciones laborales es de los sindicatos y de la patronal y que si el gobierno se metiera a ello seguramente los propios sindicatos hablarían de injerencia por parte del gobierno

al respecto pero sí que la voluntad del gobierno es intermediar intentar sentarse y buscar esos mínimos comunes además el gobierno tiene elaborado el borrador del decreto que va a articular el procedimiento para la inaplicación de los convenios colectivos que

desde su origen para todos los interlocutores sociales que han podido ir aportando y dando su punto de vista al respecto también hemos de decir que respecto al arbitraje obligatorio que se mencionaba en la iniciativa inicial

que el arbitraje como tal nos parece una herramienta válida si las partes acuerdan someterse al criterio de una o un tercero

pero no nos gusta la obligatoriedad impositiva en ninguna de sus formas tampoco en esta

en un pleno anterior decíamos que consigamos que dichos árbitros sean nombrados de común acuerdo defendemos el marco vasco de relaciones laborales para que posibilite que se conforme un espacio en el que la interlocución social de la comunidad autónoma

acuerdos válidos refrendados por ella misma por la propia sociedad para esto hay que participar se trata de trabajar conjuntamente

en lo que debe ser la voluntad y la autonomía de las partes vamos a evitar la recentralización que usted decía señor matute que

sobre esta cuestión en un pleno anterior decíamos vamos a intentar que no sea españa quien solucione los problemas surgidos aquí con los convenios colectivos

negociar vamos a dialogar vamos a consensuar dentro de nuestro marco dentro de euskadi para que ello no ocurra pero evidentemente tampoco creemos

en mi primer intervención eta amaitzen dut no creemos en los vetos ni en esto

creo que no voy a agotar el tiempo porque se lo decía en mi primera intervención

son los mismos que en otras ocasiones y como estoy convencida de que no va a ser la última vez que debatamos de este tema en esta cámara

que reiterar en otras ocasiones mire lo de la referencia sindical no lo dije yo lo dijo el señor itxaso que sin que sirva de precedente

estado bastante de acuerdo con su intervención de hoy que normalmente solemos estar en bastante desacuerdo nosotros no tenemos referencia

ni a ninguna asociación empresarial nosotros tenemos de referencia a los ciudadanos que son los que nos votan a nosotros y los sindicatos deberían de tener de referencia a los trabajadores

porque quien vota a los representantes sindicales son los trabajadores no el conjunto de los ciudadanos

es nuestra referencia pero los sindicatos no lo tienen y me voy a remitir a una prueba

la mayoría sindical de este país hizo una huelga general una huelga general política porque ahí no estaba defendiendo ningún derecho laboral que todavía no había podido ser conculcado por el gobierno del señor patxi lópez porque llevaba dos días simplemente porque no le gustaba ese gobierno

representación de los trabajadores pues oiga

con relación a lo del alcalde de orduña le voy a leer lo tengo aquí

cuál fue la justificación que dio a esos despidos el señor carlos arranz señaló

la exigencia de reducir los gastos de personal en un cinco por ciento no ha habido más remedio que llevar a cabo los despidos por la maltrecha situación económica del ayuntamiento y por el sobredimensionamiento de la plantilla municipal

cualquiera que no sea un alcalde de bildu lab y bildu pondrían el grito en el cielo porque esto sería en palabras de usted que le encanta una defensa del capitalismo pero

consejos vendo que para mí no tengo y usted no ha explicado el marco de relaciones laborales

si cuando hay instrumentos de negociación ustedes no van

no van su sindicato de referencia y ustedes lo que piden

porque se lo ha dicho aquí el señor itxaso ustedes son los representantes de la voluntad de todos los vascos de todos

el resto no tiene opinión propia y entonces ustedes deciden cuándo en un marco de relaciones laborales cuándo en una mesa se dan las condiciones para poder ir

sentarse en un instrumento de negociación y de conversación es libre y nadie dialoga si uno quiere a nadie se le puede obligar a sentar a dialogar

ya no solamente es que ustedes no van y dicen que determinados no vayan sino que es que encima quieren que la mesa no se reúna es decir que los demás tampoco vayan

ustedes hacen de la parte del país que representan

ustedes se hacen los representantes de la verdad en esta cámara solo sus posiciones son las correctas cuando algún otro grupo se queda solo ustedes le critican la soledad en este momento que los que se están quedando solos son ustedes ustedes la reivindican

la verdad es que ya se lo decía ustedes en esto como en todo no están ni por el diálogo ni por la negociación

gracias señora presidenta

esta intervención como finalicé la interpelación que hace dos semanas hice a la consejera y que ha dado lugar a esta moción señalando que una moderna red de transportes es uno de los principales indicadores de progreso de desarrollo de evolución

que si queremos coger el tren de la modernidad no debemos dejar aparcada en cocheras la ampliación del metro además

por el fomento del transporte público y sostenible como dije en ocasiones transmitimos la sensación a la ciudadanía de que la apuesta y el compromiso por la sostenibilidad se queda en un simple eslogan político a todas luces decorativo pero que no responde a un compromiso verdadero a favor del transporte público y sostenible y si queremos

y de atascos debemosofrecer alternativas reales al uso de medios de transporte contaminantes que en muchas ocasiones colapsan nuestras ciudades por tanto del metro de bilbao representa una apuesta estratégica por un transporte limpio seguro y sostenible cuya importancia no estimamos necesario reiterar

como dije aquí en ese momento de la interpelación la línea tres del metro

en bilbao hay vecinos de barrios que se sienten históricamente desatendidos como los vecinos de rekalde o los vecinos o también los setenta mil vecinos de los barrios bilbaínos de txurdinaga otxarkoaga zurbaranbarri y uribarri

este grupo en su día propuso una línea que unía otxarkoaga con rekalde pero finalmente

y se decidió que el trazado de la línea tres del metro ocupará las vías de euskotren y

pero aunque no fuese la línea que este grupo que el grupo popular quería

porque como decía supone conectar determinados barrios de bilbao históricamente desatendidos con el centro de la villa y con el resto del territorio histórico supone traer no solo físicamente sino también socialmente la conexión

las principales ciudades europeas disponen de redes de metro muy amplias en españa madrid y barcelona sin ir más lejos cuentan con redes de metro que vertebran toda la ciudad y atienden y conectan a todos los barrios por ello

queremos ser referentes queremos ofrecer una red de transportes que se vaya acercando a los parámetros de las principales ciudades europeas o a otras ciudades del resto de españa la ampliación del metro se antoja imprescindible si queremos ser punteros y ofrecer una imagen de modernidad y de vanguardismo

no puede sufrir más retrasos y dilaciones en el tiempo y la línea esta línea de metro la línea tres es el paradigma del retraso y de la dilación dos mil doce

y ahora dos mil diecisiete la verdad es que esta línea es como los oasis en el desierto un espejismo que se persigue y se persigue

cuando se puso la primera piedra se dijo que finalizaría en el dos mil doce y cuando en principio tiene previsto el gobierno su finalización en el dos mil diecisiete es decir cinco años más tarde de lo inicialmente previsto y mientras tanto los vecinos

soportando obras estamos en dos mil trece año anunciado también en alguna época como de finalización de la obra pero dos mil trece

de bilbao les diré que son las bocas de metro como decía fosteritos van a ver poco pero zanjas todas

numerosas porque numerosos han sido los ruidos las grietas los desperfectos y las pérdidas para muchos comercios y bares

tan cuantiosas que algunos incluso han tenido que cerrar la persiana parece eso si por las últimas noticias que este año lo único que va a finalizar

van a poder ver abiertos espacios públicos que actualmente se encuentran vallados

de la obra también tenemos esa desviación de más de ciento cincuenta millónes

ha explicado porque la explicación ha sido muy difusa y no estamos hablando de un desvío menor creemos que una inversión tan importante como esta requiere compromiso requiere seriedad y requiere rigor y todo ello ha faltado durante estos años al igual que tuvimos que ver esa pelea de gallos entre la diputación foral de bizkaia y el gobierno vasco en el tema de lanzaderas de galdakao a etxebarri

también hemos tenido que ver como esta infraestructura esta línea tres

conjunta era objeto de pelea más propia de un patio de colegio que de instituciones serias nadie

nadie se ha responsabilizado porque el presupuesto de la misma se haya doblado y nadie

más que cien millónes de los doscientos setenta y siete previstos y digo que nadie se ha responsabilizado porque las culpas

y además para que los vecinos no dejasen de recibir buenas noticias en la presentación de los presupuestos para este ejercicio dos mil trece se encuentran con que el actual gobierno vasco

lo que señala es que va a reprogramarla y reorientarla aunque más allá

que hay una fecha de finalización nueva que es el dos mil diecisiete

de ejecución a la disponibilidad de recursos existentes tampoco se nos explicó con exactitud qué quería decir esa reprogramación y reorientación porque lo que sí se pudo ver eso sí con exactitud es que la obra en un momento determinado se paró que después

empezaron a llevar un ritmo más lento y que los propios vecinos

y desde luego lo dijimos aquí parecía o parece que para el partido nacionalista vasco no era una prioridad no era una apuesta porque la cantidad asignada

pero eso sí los responsables de eusko trenbide sarea señalaron que con más recursos económicos se podría ir más rápido y era necesario hacer todas estas consideraciones

ahora tenemos una nueva oportunidad de que esta inversión acelere sus ritmos de ejecución

antes de lo previsto tenemos una oportunidad de tener más recursos como dije aquí a la señora consejera tras la decisión de la unión europea

queda por saber es verdad cuánto va a ser el margen de ese déficit adicional del que va a disponer euskadi

y por ello euskadi también va a tener mayores fórmulas de financiación vamos a poder disponer de más recursos públicos para poder hacer frente a esta inversión pública y ese margen de financiación

luego la otra pata del convenio la otra pata que invierte en esta infraestructura también va a tener posibilidad de incrementar la aportación

el gobierno vasco y la diputación van a tener margen para

y desde luego en este momento apostar decididamente por esta infraestructura de interés social y generadora de empleo ahora sí una cuestión de voluntad política hemos conocido que fruto de la reunión entre el lehendakari y los tres diputados generales surgió un acuerdo que contenía tres ejes uno de los cuales era la creación de un fondo de reactivación económica y parece que en ese fondo de reactivación económica puede caber incrementar la financiación de la línea tres del metro con el objeto de que los ritmos de la obra se aceleren y los vecinos puedan ver acabada

antes de ese lejano horizonte del dos mil diecisiete como decía ahora

destinarlo a una u otra cuestión y como decíamos apostar por esta inversión

es apostar no por el cemento es apostar por las personas es

es apostar por esas personas que van a poder ser empleadas

por ello nosotros presentamos esta moción y a la que se ha unido una iniciativa que existía inicialmente del partido socialista que lo que pedía era una aceleración

de los plazos de la finalización de la obra y finalmente hemos llegado a una

transaccional entre cuatro grupos desde aquí quiero dar las gracias a todos al partido socialista a upyd y al partido nacionalista vasco que gracias a su colaboración ha sido posible llegar a esta enmienda transaccional en la que además de nuestro objeto inicial que era aportar parte

se piden garantizar esa financiación suficiente también se insta la firma de ese convenio ya para la finalización de los trabajos necesarios y también

y que se refleja también en la enmienda que es que en la medida de lo posible

creo que es un gran acuerdo creo que el acuerdo es importante

sea ejecutado por el gobierno vasco porque como decía la apuesta por esta línea tres además de ser una apuesta estratégica y de futuro es una apuesta

egun on guztioi efectivamente el grupo socialista tenía también una iniciativa respecto

de que se cumpliera el plazo de a finales de dos mil quince

que es perfectamente posible incluso hoy pero hemos llegado a una transacción lo cual me parece más importante que una amplia mayoría de esta cámara apueste por que se acaben las obras aunque sea un plazo un poquito más allá del que nosotros creemos

porque lo importante es el impulso político a una obra imprescindible para bilbao muy importante para bizkaia y sobre todo para más de setenta mil personas de unos barrios que van a encontrar solución a una

que tienen desde que se construyeron desde que se crearon ex proceso

de bilbao que no tiene demasiados años pero ha estado siempre apartada del eje de comunicación y económico de la ciudad

y con una gran acumulación de personas gracias a un gran activismo de la asociación de vecino a iniciativa del partido socialista que

de esos barrios pero es verdad que esta línea tres facilita dos cosas muy importantes desde el punto de vista de los barrios que es el entronque el formar parte del eje económico del gran bilbao directamente y una comunicación directa

y entrar en la malla de toda bizkaia mediante el metro y

desde el punto de vista de la creación de empleo en una época en la que el paro sigue aumentando precisamente por desinversiones por recortes la inversión pública es la

de un impulso básico a la creación de empleo esta es una inversión pública muy importante de mucho dinero que está en marcha que está preparada para seguir el ritmo que tenía la legislatura pasada y debemos impulsarla por el bien de los vecinos por la mejora de las comunicaciones en bilbao pero por una generación de empleo mucha falta y que para eso cumple un papel fundamental la transacción que hemos alcanzado tiene

alguno es verdad que hemos admitido que se pueda acabar antes de que finalice el dos mil dieciséis bien está porque lo importante es

y ya podía ser una situación aparte de innecesaria insoportable para los vecinos que es verdad que han sufrido no solo en molestias

del barrio sino en perjuicios comerciales el efecto del retraso de las obra es verdad que el lehendakari

de los posibles fondos que puedan llegar de la relajación del cumplimiento del déficit a la línea tres de metro bilbao eso a nosotros nos sirve para saber que

se ha comprometido públicamente a destinar un dinero pero no sabemos todavía si losplazos se van a reducir que es posible y además nosotros estamos convencidos de que venga o no ese dinero

para seguir el ritmo que había en la legislatura pasada que además estaba comprometido había un crédito de compromiso previsto en el dos mil doce

y sin embargo ese crédito se ha reducido a mucho menos de la mitad es un incumplimiento de un crédito de compromiso

presupuesto y hay un matiz muy importante en el acuerdo alcanzado de que independientemente de que el gobierno vasco

eso no entorpezca de ninguna manera la reactivación

en que avancen las obras porque por discutir un convenio no vamos a seguir parados como llevamos estos cinco meses que las obras están prácticamente paralizadas

cinco meses con las obras prácticamente paralizadas y no es necesario un convenio primero porque con una al que hay basta segundo a parte

lo que quieran plasmar de nuevo en el convenio exige una tramitación parlamentaria y un plazo

que el convenio firmado para estas obras no ha agotado la ejecución de los fondos previstos en él

independientemente de que se haga un nuevo convenio para acabar las obras que falten pero no nos paremos

solicita formalmente al gobierno que mañana mismo reactive los trabajos con el dinero pendiente de ejecutar del convenio

pero que avancen las obras sin pararse recuperar el ritmo de las obras se ha hablado por al señora llanos de que no se sabía a qué se debía el retraso en las obras

también apareció ese asunto y entonces quiero hacer algunos comentarios de por qué se han retrasado las obras porque es bueno

el asunto como ustedes saben en diciembre de dos mil ocho se firmó el convenio entre diputación foral de bizkaia ets y con el gobierno vasco para

económica de las obras con una periodificación que llegaba hasta dos mil doce en ese convenio se estipulaban ciento cincuenta y tres coma seis millónes en total para la línea tres

por el informe que tenía de previsión de obras cuantificado que existe en el gobierno y por la relación de proyectos que ya tenía

a falta de cuatro por cuantificar ya sabía que le iba a costar cuarenta y seis millónes más doscientos millónes y no le dijo nada a la diputación foral en octubre de dos mil nueve

después con todos los proyectos principales redactados el gobierno sabía que el coste total en aquel momento serían doscientos treinta y uno millónes

y no le dijo nada no olvidemos que estamos hablando

pero eso fue así es decir la diputación no sabía el coste de las obras el gobierno sí y no se lo dijo

se lo dijo a la señora ardanza y consta en las actas de la comisión de seguimiento vamos a ver porque se han retrasado estas cosas en dos mil ocho que había previsto dos millónes no se ejecutó nada

se incorporan supongo a la ejecución futura en dos mil nueve

se ha ejecutado nada pero bueno cuando está en funciones aún el gobierno se licita un proyecto pero lógicamente ese año el ritmo de las obras tiene que ser más bajo porque

para avanzar en los trabajos dos mil diez y dos mil once velocidad de crucero intensificación de los trabajos un ritmo fuerte en las obras

la mitad que le correspondía de lo que se ejecutaba en esos años sin ningún problema con el gobierno socialista pagando la otra mitad pero en dos mil doce

no va a acudir a pagar la ejecución prevista para ese año

seguir con trabajos intensos no se había ejecutado hasta esa fecha lo que se tenía que haber ejecutado y decidió que solo pondría la mitad de lo previsto en el convenio para ese año seis coma siete millónes ante esto el gobierno

por falta de financiación ejecutando veinticuatro coma tres millónes aún así y tuvo que poner de su parte

que la diputación foral debe si no ha regularizado a día de hoy que lo desconozco esos cinco coma cuatro millónes en fin lo más importante de este repaso que no quiero que sea exhaustivo pero es para situar por qué han ido ralentizándose las obras

treinta y dos coma cuatro millónes por aportar de lo previsto en el convenio por eso decía yo y al gobierno vasco parecido los cinco coma cuatro millónes menos por eso decía yo que hay previsto acordado en el convenio firmado entre las dos administraciones para seguir hoy mismo con las obras porque además están todos los proyectos redactados

todas las estaciones hechas todas las cavernas absolutamente está todo falta simplemente

como remozar la estación del casco viejo para la interconexión y algún detalle más que la propia consejera en respuesta al parlamentario socialista señor zaballos el diecinueve de abril dice claramente

y el que más tarde acaba casualidad acaba antes del dos mil quince es decir

debería estar dispuesto porque en el convenio está recogido y la vez si fuera necesario hágase el convenio hágase una hagan lo que quieran pero no paren las obras

en el dos mil dieciséis fíjense que este dinero que falta por ejecutar del convenio daría para un trabajo a un ritmo fuerte de año y medio aproximadamente de sobra

para terminar ahora mismo hay cien millónes ejecutados cierto

es para remates liquidaciones y eso se puede pagar en el año siguiente de acabar las obras para acabar las obras

es decir que cada administración tendría que poner dieciocho coma ocho millónes empezando por este durante cuatro años para acabar en el plazo que pide la transacción que hoy acordamos aquí el gobierno puede tiene un presupuesto prorrogado

las modificaciones presupuestarias para incluir lo que falta y digo incluir lo que falta porque la diputación

porque a manifestado la voluntad de avanzar

en su presupuesto para la línea tres cinco millónes y son necesarios

el gobierno vasco tiene que aportar algo más pero

para llevar el ritmo suficiente para acabar las obras

solo pido

cómo están las obras la posibilidad de acabar y a qué se debe

que bildu acompañe también con su voto positivo a esta iniciativa que busca lo que buscamos todos creación de empleo mejora de las comunicaciones

amplia con el resto de bizkaia y del eje económico principal del gran bilbao que los comerciantes

puedan realizar sus actividades normales ya con comodidad y sin el perjuicio que están sufriendo por los retrasos de estas obras y no hay pretextos

con gran fuerza y se acabe y solo añadir que la línea cuatro del metro está ahí

la línea cinco vamos a completar las inversiones de bizkaia con sensatez acompasados a la realidad económica pero pensando siempre que la inversión pública además

sí gracias presidenta de manera breve no me voy a

ni a sus aspectos más técnicos creo que ya lo han hecho profusamente los

creo que lo han explicado perfectamente nosotros únicamente tenemos que decir que efectivamente pensamos que

de bilbao y la línea tres en concreto es una gran infraestructura que nosotros apoyamos y que nos parece necesaria nos parece un gran proyecto

muy útil para los ciudadanos de los barrios

asumible y que tiene todo el sentido y por lo tanto ahí estaban también nuestras enmiendas ahí está la firma en la transaccional que finalmente hemos firmado

todas las inversiones públicas que se puedan plantear aunque creen a corto plazo empleo nosotros creemos que hay que analizar bien cuáles son aquellas inversiones públicas que se plantean lo que pueden significar para el conjunto de los ciudadanos y siempre teniendo en cuenta las dificultades presupuestarias

en función de las obras que se debatan y que se plantean por decidir nuestro apoyo o no en este caso lo apoyamos lo apoyamos creo que sin ningún tipo

son distintas pero que básicamente defienden lo mismo una enmienda a la moción planteada por el grupo popular otra enmienda planteada al grupo socialista en las que básicamente décimos que este servicio de metro pueda ponerse en marcha cuanto antes normalmente no solemos señalar plazos que además presumiblemente vayan nuevamente a incumplirse para qué vamos a engañarnos posiblemente este plazo

en esa enmienda transaccional no pueda cumplirse nosotros lo que décimos es que efectivamente es una obra

nosotros la apoyamos debe hacerse obviamente cuanto antes pero no podemos olvidar cuáles son los recursos que tenemos

retrasado en el tiempo y se ha pospuesto en fin me imagino que algo habrá tenido que ver

y la crisis económica por lo tanto hay que actuar también con realismo y no podemos engañar a los ciudadanos en fin que los recursos son

la versión del señor reyes haya sido distinta en el sentido de que esto pueda hacerse rápidamente y sin ningún tipo de problema nosotros pensamos que los recursos

son limitados y por lo tanto es lógico pensar que puedan producirse retrasos pero a nosotros estos retrasos no nos parecen

ya digo ahora efectivamente vamos a tener la posibilidad de tener más recursos utilicemos parte de esos recursos a estas obras está bien así debe hacerse

finaliza para el año dos mil dieciséis lo veremos posiblemente no pueda cumplirse a nosotros no nos parecerá

sí pedimos que se pueda hacer cuanto antes siempre teniendo en cuenta qué es lo que interesa al conjunto de los ciudadanos

pero también hay otras necesidades que tienen los ciudadanos en el día a día y todo ello hay que tenerlo en cuenta

y a raíz de la interpelación planteado por la señora llanos la consejera de medioambiente y política territorial señora oregi dejó bien claro utilizando sus palabras nítido e inequívoco

e incluso nos manifestó que la apuesta del gobierno será que parte de esos posibles créditos extraordinarios fruto de la relajación en el cumplimiento del déficit público

al hilo de lo que plantea usted en la moción señora llanos bizkaiko foru aldundiko ordezkariak gauza bera

hain zuzen ere como se ha comentado aquí se está trabajando

en el plan interinstitucional promovido por el lehendakari con las diputaciones forales con el objetivo de dedicar esos posibles recursos extraordinarios al impulso de la actividad económica a la creación de empleo y al mantenimiento y mejora de la calidad de vida de la ciudadanía

al que se destinará una parte de esos nuevos recursos públicos llanos andrea eta reyes jauna ez zalantzarik izan

el veintiséis de diciembre del dos mil ocho para la construcción y financiación de la línea tres del ferrocarril metropolitano de bilbao línea etxebarri matiko en este convenio ambas instituciones en su exponendo primero consideran prioritaria la construcción y puesta en servicio la línea tres

del ferrocarril metropolitano de bilbao y el objeto de este convenio es establecer los términos en los que se llevará a cabo

como se ha comentado aquí en el mismo se establecía de forma cautelar y estimativa una financiación plurianual que ascendía a algo más de ciento cincuenta y tres coma cinco millónes distribuidos en cinco anualidades desde el dos mil ocho hasta el dos mil doce

la financiación de la construcción de la nueva infraestructura hay que decir que de esos ciento cincuenta y tres

poco más de cien lo que supone el sesenta y cinco coma cuarenta y uno por ciento y se han realizado distintas modificaciones presupuestarias

de casi doscientos ochenta millónes de euros estando agotado presupuestariamente ese convenio de diciembre de dos mil ocho se ha firmado un nuevo convenio transitorio con fecha veintiuno de marzo del dos mil trece donde básicamente se establece en primer lugar la resolución de mutuo acuerdo del convenio de dos mil ocho

y fijando a corto plazo los criterios a seguir respecto a los expedientes de contratación y expropiatorios no concluidos con una estimación como comentó también la consejera en su comparecencia de que en el ejercicio dos mil trece se necesitan veintitrés

actualmente en marcha y que se han de financiar al cincuenta por ciento

estableciéndose también que si esas cantidades estimadas para el dos mil trece fuesen mayores se financiarán igualmente al cincuenta por ciento

antes del quince de septiembre a formalizar un nuevo convenio de colaboración

con respecto a las obras presentes y futuras hasta la finalización de las mismas

es por ello que nuestras enmiendas las enmiendas de eusko abertzaleak iban en el sentido de en primer lugar reconocer y apoyar la necesaria colaboración interinstitucional

para la financiación conjunta de las obras de la línea tres del metro si bien es cierto que hay que reconocer que ha habido momentos en que dicha colaboración no ha sido tan efectiva como debiera sin entrar a valorar la causa cada uno tendrá su versión de lo ocurrido y aquí hemos escuchado una parte de una versión

desde el dos mil ocho al dos mil doce tal y como se recogía en el convenio firmado

las cantidades previstas en dicho convenio y ha pagado todas las certificaciones que se han pasado si bien es cierto como decía el señor reyes que en dos mil doce se hizo más ejecución de obra de la prevista en el convenio no sé si tuvo

anticipadas y por ello se solicitó por parte de diputación una reunión política para la modificación del convenio pero no fue posible y por tanto la diputación

ello no quita para que asuma esa responsabilidad en segundo lugar instábamos al gobierno vasco a suscribir con la diputación foral de bizkaia un nuevo convenio de colaboración para la construcción y financiación

la puesta en servicio de esta línea lo antes posible y finalmente instábamos a ambas instituciones a seguir destinando en la medida de lo posible recursos públicos a dicha línea a fin de poder realizar

por lo tanto y vistas las enmiendas planteadas entendíamos que nuestro planteamiento encajaba bastante bien

de corrección del déficit público a la partida presupuestaria prevista para la ejecución de la línea tres de metro bilbao compromiso expuesto por la señora consejera en esta misma cámara el pasado diez de mayo y la previsión del gobierno

se trata de compromiso seriedad y rigor que se debe exigir a los políticos gestores del dinero público también decirle que el proyecto de presupuesto dos mil trece como se dijo a pesar de que había

especialmente activo respecto a las obras de la línea tres del metro si bien también queremos aprovechar la ocasión para instar al grupo popular a que haga las gestiones oportunas creo que alguno lo denomina en cocina con el gobierno de su partido en españa para que en la determinación que realice del margen de ampliación del plazo de las comunidades autónomas

a los que han cumplido los objetivos marcados respecto a la enmienda presentada por eh bildu

les darán cumplida información de las modificaciones llevadas a cabo en las obras de la línea tres del metro aunque quizás quien mejor lo podría explicar

el punto tres es más o menos lo que estamos planteando en la enmienda transaccional la firma de un nuevo convenio de colaboración con un nuevo plan económico financiero real

a fin de trasladar a los vecinos y vecinas afectados unos plazos reales y serios y finalmente el punto cuatro

el de evitar las molestias algunas medidas sabemos que se han tomado por ejemplo en la calle artemisa se minimizó su ocupación pero parece que por las quejas

es que actualmente la dirección de obra de eusko trenbide sareak junto con el ayuntamiento de bilbao a través de la junta de distrito que es la forma más directa de acceder a los vecinos

y adoptando incluso medidas en base a las peticiones de ellos es evidente que las obras causan molestias y que unas obras de esta magnitud y duración en el tiempo más y compartimos el que hay que tratar de aminorar lo más posible las mismas

y he dejado para el final la pnl planteada por el grupo socialista

responsables y realistas vuelvo a repetir las palabras expresadas por la señora llanos compromisos seriedad y rigor no podemos engañar a los vecinos

no podemos poner fechas que son irreales inicialmente planteaba la inauguración en el año dos mil quince algo que materialmente es imposible

del dos mil dieciséis por lo tanto cuando menos es curiosa su proposición no de ley

no han sido capaces de llevar a cabo tal y como estaba previsto tal y como estaba previsto

millónes y medio no vamos a hablar de los doscientos setenta y siete lo que sí le puedo garantizar que instaba usted

porque sino no terminamos ni para el dos mil treinta como me decía usted anteriormente no es necesario un convenio pues ya hemos visto que hay un convenio que de mutuo acuerdo rescinde del anterior y por tanto hay que firma un nuevo convenio en el que se determinen claramente los plazos y el plan de financiación

pero ese convenio no va a retrasar y no va a parar las obras y no solo se trata de un tema de garantizar la financiación necesaria decía la consejera que no por tener más dinero se puede hacer todo lo que uno quiere y como decía compartiendo lo que decía la representante del eh bildu señora

no se puede hacer por hacerlo más rápido hacerlo de cualquier forma y de cualquier manera y a cualquier precio por tanto

y se comenzarán las obras a comienzo del dos mil doce con un plazo de ejecución de dos años y son obras muy complicadas ya que se van a realizar en la actual estación de metro euskotren

operativa en obras para su completa transformación no creo que se deba hacer como decía la señora beitialarrangoitia de forma precipitada esta obra por otro lado tenemos los problemas ya detectados por el anterior ejecutivo de estabilización y cambio del trazado del tramo etxebarri txurdinaga y finalmente

que se licitará a comienzos de dos mil catorce por tanto y

aquí mismo planteó que las obras la planificación que estaba hecha era para poner en funcionamiento en explotación la nueva línea tres

y en aras a llegar a un consenso y no en el dos mil quince que era irreal sí que el gobierno va a poner todo el empeño para que

del dos mil dieciséis poner todo el empeño para que las obras de la línea tres se puedan inaugurar besterik gabe eskerrik asko eskerrik asko zorrilla jauna erantzuteko txandan

gracias señora presidenta la verdad es que yo después de haber llegado a un acuerdo y visto el tema pensaba casi que no iba a ser necesario

esta segunda intervención porque pensaba que dados los posicionamientos

pues el consenso o las declaraciones iban a ser diferentes de las que han sido me refiero sobre todo a bildu que la verdad

a poder decir esto pero me ha sorprendido bastante y eso sí como casi siempre desagradablemente yo al señor

públicas son posibles es cierto que a veces cuando hay problemas de financiación es necesario priorizar y ver cuáles conviene acelerar o cuáles no o cuáles no importa no acelerarlas pero nosotros creemos y usted lo ha dicho que esta es una de las que en la medida de lo posible se puede

no de cualquier forma nosotros no estamos diciendo en absoluto que se acabe de cualquier manera ni tampoco hemos puesto plazos

que es parte de esa financiación extra que podemos

a esta inversión fundamentalmente porque los propios trabajadores han dicho que si se pone más dinero se pueden acortar los plazos evidentemente hay cosas y plazos que simplemente y por una cuestión de lógica y de realización de los trabajos pues no se van a poder hacer a nosotros nos parece

que exigir responsabilidades por la gestión del dinero público claro y nosotros también creemos que hay dos cuestiones que son fundamentales un retraso en el tiempo de tal envergadura y un aumento del presupuesto de tal envergadura deben de ser explicados y se debe de dar respuesta

a dicho retraso y a dicho exceso pero lo que no sé

será objeto de otro tipo de iniciativas pero no entendemos

el marco de relaciones ahora está el modelo de gestión y qué pasa que para terminar esta obra ahora nos vamos a plantear previamente el modelo de gestión del dinero público yo creo que los vecinos

querrán exigir todas pero yo he estado con la asociación de vecinos y lo que quieren es que se acabe

sea posible acabar que sea posible que se haga bien pero que se acabe exigir responsabilidad sí que se acabe

esta inversión realmente no es procedente pero no es el caso yo creo que no es el caso en absoluto se dice

hemos pasado por una línea con las molestias de los vecinos para nada este grupo y yo personalmente cada vez que he traído aquí esta iniciativa me he referido

a las molestias y más que molestias que están sufriendo los vecinos y más que molestias y he dicho aquí en las tres ocasiones en las que he intervenido algunos casos las perdidas económicas provocadas por la obra han sido de tal envergadura que han llevado a mucha gente a la pérdida de su puesto de trabajo porque han tenido que cerrar negocios y han tenido que cerrar

no le puedo admitir que me diga que es que hemos pasado que he pasado por una línea

del problema en absoluto y yo

claro que tienen que decidirse también las juntas generales por eso este grupo también ha presentado una proposición no de norma en las juntas generales y usted dice que es que esto no se puede salvar con una proposición no de ley o sea ustedes plantean a veces proposiciones no de ley asuntos vamos de lo más variopintos por calificarlos de alguna forma y un tema tan importante no puede ser objeto de una proposición no de ley

pero desde luego los grupos políticos aquí presentes tenemos que dar nuestra opinión sobre

y ha vuelto a lo del cemento mire eso le recomiendo que si está con asociaciones del ayuntamiento o sea del municipio de bilbao

díganselo díganle que apostar por esta línea es apostar por el cemento a ver qué le contestan

y es apostar por los vecinos de estos barrios pero dígale a ellos que

por el cemento y lo decía el señor zorrilla yo creo que es cierto

que no se vuelvan a ocurrir que el compromiso la seriedad y el rigor que durante que debieran de haber estado presentes desde el inicio de verdad ahora sean una realidad pero es necesario mirar al futuro

absolutamente importante el haber llegado a este acuerdo el haber llegado a los cuatro puntos que en la medida

que el déficit esa ampliación de déficit que nos va a dar unos ingresos extraordinarios nos pueda servir para que esta obra se acelere

evidentemente un convenio que regule las cosas como tienen que ser y desde luego y por eso lo he dejado para el final reiterar que se haga con la menor afectación posible menores molestias a los vecinos que bastante mal lo han pasado durante esos tres años nosotros

y como le dije aprovechando que está aquí la señora consejera que pase
la prueba de algodón ampliamente muchas gracias eskerrik asko llanos andrea